en cascada una serie de preocupantes despidos colectivos en el sector aeronáutico

se han tramitado diversos expedientes de regulación de empleo que se han traducido en la desaparición de cientos de puestos de trabajo directos y que han afectado también a diferentes filiales de grupos como aciturri alestis itp

setenta y siete trabajadoras y trabajadores de la planta de alestis el cuarenta y tres por ciento de la plantilla casi media empresa

desproporcionado e injusto de ellos cincuenta y seis a través de despidos forzosos la mayor parte mujeres una cuestión que ya ha sido considerada discriminatoria por la propia inspección de trabajo

de este año el diecinueve de enero los comités de las empresas

se unieron contra los despidos en araba y se movilizaron conjuntamente en gasteiz para mostrar que los recortes de plantillas en el sector se estaban generalizando

el portavoz del comité de aernnova insistió en que la crisis del sector aeronáutico es coyuntural debida

y mostró la disposición de las plantillas a negociar medidas coyunturales para evitar despidos innecesarios la respuesta semanas después

ochenta y dos empleados y empleadas de aernnova se quedaron sin trabajo cincuenta y cinco de ellos mediante despidos forzosos sin que la empresa tuviera en cuenta otras opciones

o prejubilaciones se prefería destruir empleo todas las empresas del sector aeronáutico alavés

acometidas por parte de la patronal que tuvieron respuesta también en otra importante movilización el pasado treinta de enero aquí también en gasteiz más de cincuenta comités de empresa y colectivos en lucha llenaron las calles para exigir a las empresas que no se despida hasta ese momento se habían tramitado cinco expedientes de regulación de empleo que han afectado a diferentes filiales de los grupos ya mencionados aciturri alestis y aernnova con la reducción de varios centenares de puestos de trabajo directos los trabajadores

denuncian que se está aprovechando una situación coyuntural para aplicar una estrategia de ajuste sectorial llevándose por delante cientos de puestos de trabajo e importantes condiciones laborales conseguidas tras muchos años de esfuerzo

a las empresas del sector apoyo público económico que ha generado importantes beneficios para estas compañías no es una práctica

o de empresa para aplicar medidas de lo que en la jerga patronal se llaman ajustes que básicamente

estructural de las condiciones de trabajo y es evidente que la crisis del covid no está siendo una excepción desde el inicio de la pandemia venimos observando como en diferentes sectores industriales y en distintas regiones de todo el estado se está repitiendo

no es otro que el de aprovechar en muchos casos una caída puntual y coyuntural de la facturación para acometer ajustes estructurales y desplegar

una reestructuración de las plantillas que difícilmente se va a revertir cuando se reanude una coyuntura de crecimiento económico especialmente

es especialmente dolorosa además para las y los trabajadores cuando se trata de empresas que han tenido importantísimos beneficios en los últimos años en los años anteriores a la pandemia seguimos denunciando desde elkarrekin podemos izquierda unida que no son prácticas aceptables cuando se han tenido beneficios millónarios previos y cuando hay tanto dinero público también puesto al servicio del devenir de empresas

tal y como hicimos el pasado otoño en este parlamento a través de una proposición no de ley que encontró el rechazo mayoritario de la cámara el sector aeronáutico vasco no está siendo una excepción

este tipo de despidos que pueden ser evitados y que debemos en nuestra opinión desde este parlamento también empujar para que no se produzcan

que desde luego también sino para que no se pierda un capital humano de gran importancia para la industria y el desarrollo del país este sector factura unos dos mil quinientos millónes de euros anuales que representan

de euskadi y el seis por ciento del industrial

que mejor ha estado funcionando hasta la fecha pues llevaba diez años consecutivos de crecimiento hasta la llegada de la pandemia se trata por lo tanto

a preservar por la importancia que tiene para euskadi en términos económicos y de creación de riqueza y es además una industria caracterizada por empleos altamente cualificados

empleos cualificados que hacen que sea aún más importante no perder esos puestos de trabajo que ya existían

es un problema aún mucho más difícil de revertir que la pérdida de puestos de trabajo no cualificados es cierto no lo vamos a negar no vamos a ser nosotros quienes neguemos que la industria

en euskadi ha encontrado en la pandemia del coronavirus una importante crisis por la paralización de la aviación comercial

aeronáutica en euskadi es complicada eso hay que reconocerlo es cierto se está deteriorando el peso de este sector y las empresas están recurriendo a la indeseable destrucción de puestos de trabajo y merma de las condiciones laborales de cientos de trabajadoras y trabajadores pero tan cierto como esto

de una crisis claramente coyuntural temporal cuya duración no podemos prever con exactitud pero que va claramente

drástica pero coyuntural de la movilidad ligada a la aviación comercial ante esta crisis coyuntural tan específica con características tan concretas es un enorme error que las empresas acometan

la alta cualificación y la experiencia de cientos de trabajadoras y trabajadores del sector se están desprendiendo del mejor capital que tienen las y los trabajadores un error que puede suponer que lo que hoy es una crisis coyuntural acabe siendo por las propias decisiones de las empresas

la actual situación un error que pensamos que debemos criticar y sobre todo poner lo que esté en nuestra mano para que no se cometa por parte de las empresas

los que ya se han ejecutado y los que se pretenden ejecutar además de injustos son como decía un gran error estratégico a medio

porque el empleo en el sector aeronáutico es el principal capital precisamente del sector estamos hablando de un empleo

sino de un empleo de alta cualificación técnica las trabajadoras los trabajadores se han estado movilizando durante varios meses reclamando a las empresas que no apliquen

han pedido también la implicación de las instituciones vascas ante esas medidas estructurales que las empresas están acometiendo en una situación claramente coyuntural medidas que al final se están basando básicamente en despidos

de estas características pero le compete también en nuestra opinión velar por el mantenimiento de cada puesto de trabajo la parte obrera del conflicto

las posibles alternativas a los despidos la parte patronal ha preferido avanzar en cambio en la senda de la destrucción de puestos de trabajo esta crisis en este sector lo vamos a volver a repetir es totalmente coyuntural

volverán a los niveles del año dos mil diecinueve donde el sector gozaba de muy buena salud y contaba con unas excelentes previsiones

lo que dice el propio sector no solo las y los trabajadores desgraciadamente como hemos podido comprobar en los distintos procesos de regulación de empleo las empresas han utilizado estos con otros fines

los balances eliminar salarios decentes o reorganizar las plantillas de manera que poco tiene que ver con una disminución

de trabajo la iniciativa que hemos acordado hoy a raíz de la proposición no de ley que traemos al parlamento pensamos que tiene una virtualidad precisamente en ese mensaje el mensaje que se le lanza a las empresas

son las que están planteando las y los trabajadores a través de sus sindicatos de clase desde el primer día las fórmulas coyunturales temporales y no las fórmulas estructurales en forma de despido aplicando las empresas y además con un mensaje añadido la readmisión de las personas trabajadoras ya despedidas por lo tanto nosotros pensamos que hoy o así lo intentamos

en este parlamento con este acuerdo para lanzar ese mensaje claro porque creemos que las y los trabajadores del sector

hay medidas posibles para evitar todos esos despidos son las empresas las que de momento prefieren aplicar otro tipo de medidas creo que es importante

efectivamente a través de la negociación colectiva se puedan acordar esas medidas que están reclamando en este momento las y los trabajadores

la importancia que el sector aeronáutico tiene para la economía vasca ya ha quedado suficientemente acreditada en los datos aportados anteriormente creo que estamos todos al tanto de ellos es un sector tractor fundamental

añadiré que aunque el sector es importante para el pib vasco sin embargo nuestra presencia a nivel internacional es bastante reducida no tenemos ninguna empresa

y solamente disponemos de cuatro empresas con clasificación tier uno es decir los proveedores de los om certificados

a pesar de esto según hegan el sector en euskadi daba trabajo efectivamente en dos mil diecinueve

y hoy tenemos que lamentar importantes pérdidas de empleo que se están produciendo y que están afectando a muchas personas que han visto gravemente alterado su proyecto de vida

y con los que nos comprometemos a trabajar activamente para poner en marcha iniciativas que les permitan recuperar

que necesitan para volver a competir en el mercado laboral después de años de ocupar un puesto de trabajo como ya dijimos en nuestra intervención del día cinco de marzo esta crisis creemos que se veía venir de lejos porque el señor hidalgo ha insistido en su intervención anterior muchas veces en que una de las causas del problema es que es una crisis coyuntural

entonces estarían los despidos bien hechos esa es la diferencia bien nosotros realmente nosotros no compartimos

puramente coyuntural fruto únicamente de la pandemia

y esto es cierto aunque es verdad que la pandemia ha precipitado y ha agudizado la crisis poniendo de manifiesto que muchas de las empresas del sector no tenían la solidez necesaria para resistir

no nos estamos refiriendo a las conclusiones de algún analista desquiciado

como por ejemplo el fin la terminación del programa

del que se hacían herrajes metálicos del timón en berantevilla al estabilizador horizontal que hacía aernnova

itp y la multitud de proveedores del entorno que los suministraban también podemos citar la paralización de la producción del

congelando la cadena de suministro al completo de la bajada de producción

o de las dudas sobre la continuidad del programa cien doscientos noventa y cinco que llevan años soportando fabricantes como aciturri

y las trata con proveedores locales estos hechos son un ejemplo que muestra bien a las claras que la crisis del sector no es solo coyuntural repito

estructural un déficit estructural que venía de antes además a esto para completar la foto hay que tener en cuenta otro factor importante el sector aeronáutico

al resto de sectores industriales se enfrentaba a un proceso se enfrenta a un proceso de transformación y cambio acelerado muy importante debido a la necesidad de reducir emisiones a la necesidad de ajustar consumo de combustibles al cambio de modelo de transporte aéreo a la necesidad de implantar nuevos procesos productivos

y procesos superficiales novedosos entre otros cambios sin olvidar la multitud de proyectos innovadores incluidos dentro de la iniciativa europea

una de las deficiencias estructurales más claras que ha tenido nuestra industria

ha sido desde nuestro punto de vista la deficiente inversión en investigación y desarrollo que venía reduciéndose desde el dos mil once que pasó de un trece por ciento en ese año al cuatro coma sesenta y tres por ciento a pesar de que el sector había incrementado el número de puestos de trabajo

entre dos mil doce y dos mil diecinueve se habían reducido tres coma cinco por ciento

bajaban los empleados que trabajaban en investigación y desarrollo

es clave para un sector de alta tecnología como es este que en el resto de los países que son conscientes de estar en una intensa carrera por la competitividad lo que han hecho es lo contrario

algunos las han aumentado sustancialmente y también todos sabemos que invertir

ya sabemos que no son soluciones que redunden en el corto plazo pero sí en el largo plazo

como pasa siempre se ha convertido en corto y la falta de inversiones en euskadi nos ha

estructural que ha puesto en peligro a buena parte de las empresas del sector y a un gran número de puestos de trabajo

hubiéramos tenido este problema pero menor seguramente porque las empresas serían más sólidas

y cuál ha sido el papel del gobierno en este proceso bueno pues eso mismo le preguntamos a la consejera de desarrollo económico en el pleno de control del día cinco de marzo

de las cuales por cierto cinco todavía después de casi dos meses seguimos pendientes de respuesta y la señora consejera

muy potentes como son el centro de tecnologías avanzadas y el centro de fabricación avanzada

la administración vasca las diputaciones forales y el gobierno vasco invierten

en el tema pero cuando hemos recibido los datos concretos nuestra preocupación no se ha despejado

ha ascendido en dos mil veinte el año de la pandemia al cta a través del programa elkartek a la astronómica cifra de doscientos sesenta mil trescientos sesenta y cinco euros en dos proyectos

por el programa elkartek que en dos mil diecinueve y a su vez en dos mil diecinueve ya habían recibido un veintinueve por ciento menos que en dos mil dieciocho y de manera global

las subvenciones totales de todos los organismos públicos que la consejera mencionó el pasado cinco de marzo en dos mil diecinueve

por ciento inferiores a las que recibió en dos mil dieciocho todo como ustedes pueden comprender previo a la pandemia

la crisis del sector aeronáutico viene de mucho antes tiene sus raíces en un periodo anterior a la crisis del covid hemeretzi en paralelo observamos que en el programa aprobado por el gobierno vasco para acceder a los fondos de recuperación europeos a preguntas también de nuestro grupo parlamentario nos dice el gobierno que no se contempla ningún proyecto para el sector aeronáutico es decir

un sector estratégico no se le ha prestado por parte del gobierno la atención debida ni se han realizado las inversiones necesarias y por eso cuando ha llegado la crisis se ha partido por la mitad y sus empresas y sus empleos se han visto

por eso les pedimos en nuestra enmienda que defiendan e impulsen inviertan en este sector

porque es esencial para sostener el tejido productivo porque

hay que invertir en la base para que luego pueda haber un poco de edificio

apoyar la empleabilidad de los trabajadores que han perdido el empleo además porque el problema

con readmitir a los despedidos porque señor hernández las empresas no les han despedido por la maldad innata y la ambición desmedida que ve usted en cualquier iniciativa empresarial sino porque no les ha quedado más remedio y porque de no hacerlo pondrían en peligro todo proyecto empresarial afectando a muchas más personas y tampoco nos parece de recibo señor casanova lo digo por su enmienda inicial que usted pida al gobierno vasco

porque ese creemos que no debe ser el problema de la administración la administración debe velar para que las empresas puedan tener proyectos viables y debemos hacerlo antes de que se planteen

lamentablemente hay pérdidas de empleo y tejido productivo que ya no tienen remedio pero convendría mirar al futuro y si lo hacemos

tenemos una gran oportunidad para la que por cada minuto que pasa es un minuto perdido

en un polo capaz de atraer inversores internacionales en aeronáutica que generen empleo y riqueza esta es la pregunta que invito a hacernos a todas las fuerzas políticas y especialmente al gobierno vasco y con la

gracias señora presidenta buenas tardes a todos la pnl que nos trae hoy podemos y su argumentario es lo que ya esperábamos pero resulta cuanto menos curiosa la enmienda del gobierno a esta iniciativa que ahora resulta que ha sido una transaccional

tecnología empleo cualificado lo que no todas las provincias ni autonomías de españa tienen y que sin embargo ustedes parecen no tener en cuenta

no podemos decir siempre la empresa es mala y los trabajadores son buenos yo creo que hay que buscar un punto de inflexión intermedio para empezar a trabajar y para que

entre las distintas enmiendas que han presentado los grupos de la oposición hay una cantidad de soluciones dispares algunas a nuestro juicio otras más juiciosas pero todas incluida la nuestra tienen un mismo fin salvar empleos salvar la empresa y hacerla más fuerte en resumidas cuentas seguir generando riqueza sorprende ver al gobierno defender en este

en fórmulas como seguiremos dialogando les ofreceremos todo lo que esté en nuestra mano algo a lo que ya nos tienen acostumbrados el problema es que no tienen credibilidad ni para la oposición ni para los trabajadores ni para la empresa y les digo por qué ustedes quieren mantener el empleo y todos los que estamos aquí deduzco que también pero sí que tenemos el conocimiento claro y preciso de que la empresa no tuvo noticias de ningún tipo respecto a los fondos next generation nadie

nadie les informo nadie se preocupó de llamar ni preguntar para facilitarles las cosas lo que tuvieron que hacer es buscarse la vida de la mejor manera que pudieron saben cómo tuvieron que ir al gobierno de españa para poder avanzar con sus proyectos en relación a los citados fondos así defendemos nuestras empresas y así respaldamos nuestro empleo

oscurantismo y más oscurantismo algo a lo que ya nos tienen muy acostumbrados

es una empresa clave en nuestra región no podemos dejar que se desangre tenemos que potenciarla y ustedes están en la obligación de atender a sus proyectos eso que ayudará además a mantener los puestos de trabajo creemos que hay que dejar de lado las ideas faraónicas como el tav y dar prioridad a las cosas del comer

antes de que sea demasiado tarde como hemos visto ya durante este pleno en muchos casos ha ocurrido euskaltel lo hemos tratado hoy la naval lo tratamos el otro día

le pide al gobierno vasco bueno se sitúa en el marco de la negociación colectiva la resolución

conflictos laborales sabemos qué legislación laboral existe

y que asimetrías se dan en el marco de esa negociación colectiva se le permite al gobierno vasco que haga mutis y deposite

se les pide a las partes que tengan buena voluntad y se le pide únicamente al gobierno que anime a que sigan abiertas esas vías sin ninguna implicación y el señor gil vegas por ejemplo esta mañana decía que él no está de acuerdo con los bonos

también se puede decir que hay despidos que son legales con los que políticamente no estamos de acuerdo porque no son despidos imprescindibles para la buena marcha de la empresa sino que son despidos que buscan ajustar la contabilidad para provocar una mayor asimetría en el reparto

de la patronal y creo que hay despidos aquí que se están dando en ese contexto también desaparece la concepción de crisis coyuntural y no es una cuestión semántica si una crisis es coyuntural

no son las mismas que las que se pueden tomarse si una crisis es estructural y por tanto no es una cuestión de matiz

con repercusiones claras y en esta transaccional desaparece

coyuntural por tanto como decíamos nulo nivel de exigencia para el gobierno vasco que se puede poner de perfil con esta cuestión también se me hace raro además ver y esto puede ser un poco una bilbainada pero hay cosas positivas en esa transaccional que están precisamente tomadas de la enmienda

proponente ni en la de los grupos que respaldan al gobierno pero aun así enunciar

pero no añadir junto a esos conceptos una serie de responsabilidades

enunciar buenas intenciones pero realmente dejar las cosas exactamente como estaban hay dos grandes debates si la crisis es coyuntural o estructural por un lado

creemos desde nuestro grupo así lo analizamos que hay una problemática asociada a la covid

se ha dado un parón total y absoluto de la actividad y eso evidentemente no hay empresa que lo soporte sin algún tipo de ajuste y ellos nos estaban diciendo que eso sí es coyuntural

de cuatro o cinco años de parón que estaban haciendo desde el cluster o desde determinadas asesorías no van a ser tan drásticas y que por tanto va a ser una crisis coyuntural

y que por tanto hay músculo en esas empresas y músculo financiero en base a los cientos de millónes que han ganado los años anteriores para pasar esta transición

es indudable pero hay reservas en esas empresas para hacer esa transición

a casa y luego es evidente es evidente que hay otro problema que es más a medio y largo plazo estructural que es la propia transición del sector

y que es una transición tecnológica y evidentemente hay otro recorrido que hacer apostando a través de medidas que permitan al sector situarse y reposicionarse en un escenario futuro en el cual va a haber fundamentalmente cambios

una empresa que hace motores a reacción probablemente verá que no se van a hacer no en cinco ni en diez ni en quince pero quizá en veinte años no se van a hacer motores a reacción y es verdad que se van a incorporar motores eléctricos

con hidrógeno también se van a incorporar combustibles sintéticos hay una transición y habrá que redimensionar también un sector

que en algunos lugares está llevando ya incluso a prohibiciones de vuelos de determinadas distancias

a corto plazo a esa travesía al desierto asociada al desplome del mercado

en la enmienda que se va a aprobar qué aportaciones se hace a todo esto pues yo realmente veo que ninguna las empresas están aprovechando para hacer una serie de despidos drásticos y decía el señor gil que no es por maldad no no es por maldad es por dinero

porque si despiden a trabajadores con condiciones laborales buenas y con antigüedad y cuando pase la crisis contratan a gente de forma precaria

por dinero y estamos viendo cosas que realmente son denunciables

las toma en sevilla y si concentra todo el grueso de la destrucción de empleo aquí habrá que denunciarlo y si esa destrucción de empleo se concentra en las mujeres habrá que denunciarlo una empresa alestis que había sido ejemplar en la incorporación

en la liquidación de empleo femenino oiga y si resulta que alestis aparte de concentrar aquí los despidos

vinculada con los sindicatos que más se han opuesto al ere y les despide quitando los delegados que no puede les despide a todos los demás habrá que denunciarlo verdad

también habrá que denunciar la actitud policial en los piquetes cuando le rompen la cara

acción que incluso motivó la respuesta del lehendakari excepcional y es porque era un responsable sindical como en otra ocasión denunció también un exceso policial

o al de comisiones obreras los demás seguro que cuando le rompen la cara el otro día estuve con una trabajadora de tubacex que le rompieron el dedo aquí en la puerta del parlamento

kartera lapurtuko digutela decía el otro día la señora tapia que el gobierno quiere entrar en itp bueno pues entonces como dice el chiste

casi hemos entrado en itp casi hemos entrar en euskaltel casi hemos entrado en la naval

la mayor crisis de la historia de la aeronáutica que coincide con un reto tecnológico y de transición sin parangón el balance de lo realizado fuera de lo declarativo

muchas gracias señora presidenta la industria aeronáutica es para álava y para euskadi un sector estratégico de vista económico desde el punto de vista del empleo estable de calidad y de cualificación profesional y también desde el punto de vista de la proyección del territorio como todos sabemos el sector aeronáutico se ha visto especialmente afectado por las repercusiones globales de la crisis del coronavirus por su estrecha vinculación a la caída del turismo y al tráfico aéreo mundial que ha provocado importantes

y lo cierto es que más allá de perdernos en datos y cifras de negocio esta situación ha generado también consecuencias muy negativas a un buen número de trabajadoras y de trabajadores

inmersos en una situación de incertidumbre personas a las que trasladamos desde el grupo socialista nuestra solidaridad y apoyo desde el partido socialista siempre hemos lanzado un mismo mensaje que reiteramos el objetivo siempre debe ser el mantenimiento del empleo y en ese sentido cuando hemos tenido la oportunidad de escuchar a los trabajadores y trabajadoras de aquellas empresas tanto en la comisión de empleo y trabajo

desde el partido socialista siempre hemos destacado nuestro empeño porque a través de la negociación colectiva y el acuerdo las empresas y los representantes legales de las personas trabajadoras

alternativas a los despidos que permitan a las empresas afrontar las dificultades que están sufriendo y en cada ocasión siempre ha habido un ofrecimiento

pero como saben esta mediación institucional solo es posible si ambas partes lo requieren pero desgraciadamente no ha sido así hoy tenemos como he dicho al principio un buen número de personas que han perdido su empleo y procedimientos judicializados ante un escenario de incertidumbre

queremos apelar a la necesidad de buscar acuerdos con ese objetivo que tiene que ser compartido de mantenimiento de los puestos de trabajo tal y como recogemos en la enmienda transaccional que hemos alcanzado con elkarrekin podemos izquierda unida a quien agradezco

nosotros compartimos que frente a la situación que se está dando en el sector aeronáutico la receta tiene que ser adoptar medidas

el sector de forma resiliente mantener y aprovechar el conocimiento específico de los trabajadores y la adaptación a los nuevos retos que afronta el sector

es que lo es el mantenimiento del empleo y evitar la precarización de las condiciones laborales y no queremos desaprovechar la oportunidad

las empresas y la representación legal de las trabajadoras y trabajadores busquen esas soluciones alternativas a esos despidos que permitan a las empresas

que eviten despidos y posibiliten la readmisión de las personas despedidas y en ese mismo sentido instar al gobierno vasco a continuar con ese ofrecimiento que siempre ha existido y con ello a colaborar activamente para que se mantengan abiertas esas vías de diálogo porque ese diálogo entre las partes es necesario y si hay quien se cierra a ello lo contempla como un mero trámite a cumplimentar para acabar produciendo efectos tan traumáticos como de los que estamos hablando simplemente merece nuestro reproche público

proceso esa estrategia para ser competitivos a juicio de los socialistas no puede suponer la destrucción del empleo y mucho menos una destrucción de forma unilateral

así lo hemos trasladado desde el principio y en esto debemos estar y estamos todos todas las instituciones diputación foral de álava gobierno vasco y también el gobierno de españa como saben el pasado seis de abril los socialistas apoyamos en el congreso de los diputados una iniciativa de podemos

conjuntamente con el gobierno vasco en la búsqueda de soluciones alternativas a la destrucción de empleo en el sector de la aeronáutica alavesa en el mismo sentido de lo que hoy haremos aquí

asuntos de política económica estratégica asuntos de país que necesitan y tienen un ámbito de actuación que trasciende el ámbito foral y autonómico

instamos al gobierno vasco a seguir trabajando en colaboración y coordinación con el conjunto del sector aeronáutico y con el resto de administraciones públicas cada una en la medida de sus competencias y capacidad económica a fin de adoptar las decisiones oportunas que permitan a la

asumir los retos de consolidación competitividad arraigo formación

como saben el gobierno vasco viene trabajando de la mano junto con el cluster no solo a nivel de euskadi sino también a nivel estatal y europeo en el análisis y búsqueda de soluciones que pasan por la liquidez procesos de consolidación colaboración y digitalización

a darles lectura de estas actuaciones las conocen a través de las respuestas y solicitudes de información documentada contestadas desde el departamento de desarrollo económico sostenibilidad y medio ambiente

y no voy a hacerlo porque me quiero quedar con lo que la consejera tapia dijo en esta misma cámara el pasado cinco de marzo se puede hacer más sí se debe hacer más

planteando y abordando actuaciones conjuntas entre las diferentes instituciones que permitan a la industria aeronáutica asumir los retos de consolidación competitividad arraigo formación
pero con el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales dignas nada más y gracias eskerrik asko rico jauna

hacer desaparecer los efectos devastadores que ha tenido sobre el empleo el covid

lleno de matices porque la situación es compleja y porque se dan muchas paradojas se ha mencionado las cuatro empresas en las cuales se están haciendo despidos y que tienen presencia en euskadi la mitad son vascas

y aernnova y el señor casanova ha lanzado una serie de una concatenación de supuestos

despide más mujeres que hombres y si alestis recorta más empleo en euskadi

yo le hago una pregunta sabe usted que alestis tiene entre sus accionistas

sociedad española de participaciones industriales es decir la cuarta parte de la empresa es pública lo digo porque estamos

de que participar de que el que los gobiernos participen en el sector privado

y empresas estratégicas es la solución para que no se den los despidos y una de las cuatro patas es casi pública

muy grande por tanto ya digo hay muchas paradojas y es una situación compleja bueno yo por empezar un poco con tono positivo primero creo que hay que celebrar ya que al sector de la aeronáutica en estos momentos lo que más le fastidia es el tema del covid yo creo que hay que alegrarse

a vacunar al setenta por ciento en julio o adelantado dos meses la fecha objetivo para que un setenta por ciento de los ciudadanos esté

ya está haciendo porque las aerolíneas suelen programar con tres meses de antelación los vuelos suelen cerrar la programación de vuelos con tres meses de antelación y bueno ya se está viendo que va a haber o al menos programados están el doble de vuelos que el año pasado

comparando con la época precovid los vuelos de ocio van a ir recobrando el tono parece que

habrá que ver y en las dos otras patas que son la aviación comercial apenas ha sufrido

moviendo en este período y el sector militar pues depende directamente de las inversiones públicas de los estados con lo cual en los últimos dos años

ningún bajón pero estamos en una industria global

especialmente globalizada como la naval competimos en el mundo

han anunciado despidos la ventaja de hablar

relativamente reducido en número de compañías solamente hay catorce empresas de las cuales las tractoras son dos que son las vascas son aernnova e itp aero nos permite individualizar un poco y yendo una por una primero tenemos itp

la consejera tapia en el marco de la presentación del plan de emprendimiento tecnológico dejó claro que el gobierno vasco

para que no se den despidos pero bueno siempre uno tiene mejor información si está dentro del consejo de administración y eso es lo que pretende el gobierno vasco y también el gobierno español tiene ahí una labor porque tiene capacidad de veto y tiene también ese instrumento que es las epi con la que puede participar

que lo está pasando regular en este covid pero que bueno es un actor importante porque en esa fase de consolidación del sector aernnova itp aciturri también bueno pues pueden jugar un papel importante por ejemplo para tomar una participación importante

un único una única gran empresa

ser locomotora del resto de las trece que puedan ser digamos vagones que vayan detrás de esa locomotora en cuanto a cómo se ha afrontado desde lo institucional yo creo que no

fundamentales ha sido una estrategia acertada a pesar de que

el estado español ya está en el ciento veinte por ciento de deuda de su pib y algún día habrá que

cómo vamos a pagar eso y en segundo término eusko jaurlaritza el gobierno vasco tiene

no voy a alargarme dos estrategias principales el centro de fabricación avanzada en zamudio del cual forman parte

y el propio gobierno vasco y la segunda es

y cuyo objetivo es que las empresas del sector compitan de forma cooperativa dos términos que parecen oximoron pero que pueden

pueden ser complementarias tenemos que crear un entorno por tanto propicio para que las empresas sigan creciendo y sigan generando

de entre el diecisiete y el veinticuatro por ciento no sé cuál es su fuente

casi parece una anécdota parece que toda la crisis proviene de que el gobierno vasco se ha dormido en los laureles y yo les voy a hacer una pregunta a todos los compañeros parlamentarios se acuerdan de la última vez que vieron una estela de avión en el cielo

y si no hay vuelos no hay desgaste de aviones no hacen falta suministros para repararlos y desde luego las compañías aéreas bajan su pedido

y voy a dar un dato interesante hoy ha anunciado que ha ganado trescientos sesenta y dos millónes de euros que es un dato que los trabajadores deberían poner en la mesa

pero el número de pedidos este primer trimestre ha bajado de trescientos cincuenta y seis esta es la situación y por tanto de anécdota nada lo están pasando canutas y todos entendemos por qué

en el discurso de coyuntural o estructural yo digo una cosa los balances no entienden de discursos políticos de matizaciones parlamentarias

el plazo de afectación y ver cuánto dinero hay en caja para hacerle frente y conforme a eso

por parte de nuestro grupo a la empresa que sea responsable y que trate

de despedir a cuanta menos gente mejor primero para mantener su capacidad productiva y segundo para que las medidas no sean traumáticas

siempre también hay que pedirle a los trabajadores y a los sindicatos que tengan una actitud favorable a la negociación que en este caso en la mayor parte de los casos y los hemos tenido aquí los hemos

en este mismo parlamento pues lo han tenido no ha sido

discurso en fin con matices enpresaren bideragarritasuna kolokan jarri gabe

y acompañándolas en la generación de empleo futuro tratando

humano posible para ello hay una sola clave la negociación colectiva en el seno de las empresas

industriales de medio plazo el gobierno va a seguir trabajando en las dos claves

de fabricación avanzada y en el seno del clúster hegan y formando parte también de ese elenco de actores que van a tratar de consolidar el sector aeronáutico vasco para darle músculo

en futuras crisis con la misma fortaleza eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos

bai eskerrik asko efectivamente la iniciativa original que registramos es la misma que llevamos al congreso de los diputados a la que ha hecho referencia

generales de araba porque fundamentalmente lo que busca la iniciativa es lanzar un mensaje claro

a las empresas más allá de la fórmula final de la redacción

medidas coyunturales frente a esas medidas estructurales que están siendo los despidos

claramente las empresas del sector que esto es lo que venimos escuchando a las y los trabajadores y que además en nuestra opinión han demostrado con datos en todo este tiempo y que les hemos podido escuchar también

en este parlamento esto se ha recogido en la transacción y desde luego mi grupo pensamos que no podíamos

oportunidad de que se lanzase ese mensaje desde este parlamento el mensaje que venimos oyendo repetir una y otra vez las empresas están aprovechando una crisis coyuntural muy ligada a esa caída de los vuelos para aplicar medidas estructurales y por lo tanto el mensaje es que esas decisiones son un error y que se deben adoptar medidas coyunturales

y que además en este momento porque ya se han aplicado un montón de despidos se posibilite la readmisión de los despedidos ciertamente a través de la negociación colectiva

porque evidentemente los trabajadores ya han dicho que están de acuerdo o que han planteado una serie de medidas en esa línea que

las que están justificando las medidas que toman en base a la argumentación de que es una crisis estructural por eso yo no creo que es baladí ese debate entre si es una crisis coyuntural o una crisis estructural yo puedo coincidir con el señor

casanova en la crítica a la actuación

en concreto pero para nosotros ese debate sobre si es una crisis estructural o coyuntural no es baladí porque sobre todo detrás de esta iniciativa lo que nosotros buscamos es ese mensaje concreto muy a corto plazo no traíamos un debate sobre políticas no traíamos un debate sobre la política respecto a la aeronáutica lógicamente hay que hablar de eso pero lo que nos interesaba es sobre todo que esos despidos

que este parlamento pueda señalar de alguna manera que son un error que son injustos y que son las medidas contrarias las que deberían aplicar las empresas porque es verdad tenía razón el señor casanova faltarían muchas cosas lógicamente en un debate como este

en la transacción a la que hemos llegado con los grupos que sostienen al gobierno y faltan muchas cosas en una iniciativa original que nosotros hemos traído

en el resto de enmiendas por supuesto también por la actuación de la ertzaintza que todos hemos visto pero para nosotros y ahí

es ese mensaje que entendemos que no es tampoco un mensaje cualquiera

de que las medidas que se tienen que tomar no son las de los despidos y que además

a las y los trabajadores porque

yo creo que la vería venir usted porque desde luego cuando estuvieron aquí los trabajadores nos expusieron

desde luego así que nosotros por lo tanto pues nos vamos mínimamente satisfechos con este acuerdo sobre todo por ese mensaje

que están cometiendo despidos injustos y despidos innecesarios y sobre todo la necesidad también de la readmisión de las personas que ya se han quedado en la calle muchas de ellas

gracias señora presidenta antes de nada señor hernández

pero no consigo encontrar en la transacción que han hecho ustedes ninguna referencia a

en todo caso reconozco que esta

esta propuesta ha puesto de manifiesto encima de la mesa algo que creo que todos compartimos y es que

que es estratégico que es motor que es el sector aeronáutico y que está claro que no se le ha prestado la atención necesaria entre otras cosas por su capacidad de dar empleo pero no solamente por eso sino también porque efectivamente tracciona

pero tarde como siempre tarde cuando ya las cosas no tienen remedio lo mismo que nos ha pasado con la naval lo mismo que nos ha pasado con euskaltel tarde y ahora pues repito está bien que hablemos de esto porque así igual

pero yo particularmente creo que deberíamos de pensar en el futuro por cierto me

el propio clúster y además está en mostré aquí el gráfico lo tengo ahí también

hablamos de esto con la consejera decía que no obstante prefiero centrarme en el futuro porque creo que es realmente lo que importa es realmente a lo que vamos es decir

de aquí a los siguientes años para que esto no vuelva a pasar esa es la pregunta del millón qué vamos a hacer para apoyar y para fortalecer de verdad

vasca y a todo su sector qué vamos a hacer para

qué vamos a hacer para conseguir atraer inversiones internacionales porque este sector necesita mucho capital

potentes es decir qué tipo de medidas vamos a tomar para modificar nuestro ecosistema nuestro ecosistema económico para que este

qué vamos a hacer para apoyar eficazmente a las startups pueden nacer o para que nazcan más en este sector

qué vamos a hacer para apoyar a los centros de referencia que hemos hablado y que luego vemos con datos que realmente

qué vamos a hacer para capacitar de verdad a trabajadores especializados que es uno de los elementos de atracción fundamentales

qué vamos a hacer para disponer de especialistas en aeronáutica que nos pongan como referente en el mundo es decir qué vamos a hacer en el futuro

porque lo que nos ha pasado ya no tiene mucho remedio y

en los que ya los trabajadores están despedidos las empresas están debilitadas el sector está en crisis profunda ya poco podemos hacer entonces pensemos en el futuro y anticipémonos a lo que va a pasar antes de que llegue porque si no

sobre lo de llegar tarde en parte de acuerdo y en parte no a veces usted me recuerda un poco al que llega dos horas tarde al cine entra y ve que en la pantalla pone the end

la naval tiene un recorrido parlamentario de decenas de iniciativas

y de euskaltel en su recorrido parlamentario pero esto se ha trabajado

esta iniciativa yo creo que sí llega ciertamente tarde porque ya es un poco a toro pasado

de economía que hay una de las que más me gusta es aquella que dice que la economía es la ciencia que predice el pasado

para no sé exactamente muy bien qué porque los despidos se han producido

y nosotros creo recordar que si no fue en el primer pleno de esta legislatura mucho no le faltó para que trajéramos ya la pregunta a la consejera con respecto al futuro del sector aeronáutico pregunta que volvemos a reiterar

al futuro de aernnova y que por tercera vez volvimos a traer con respecto a la venta de itp y al posible interés de algún grupo vasco en su compra

pero es verdad que remitirnos ahora a la negociación colectiva me parece un poco tardío sobretodo sabiendo como decía el señor

la estructura de la negociación colectiva como un trámite y a partir de ahí no está intentando realmente buscar soluciones sino que ya tiene predeterminado que va a despedir a x número de gente usted señor rico ha dicho eso se merece el reproche público pues lo estoy esperando

un reproche público a ese tipo de prácticas porque realmente cuando hablábamos de la crítica a la gestión en euskaltel o cuando podemos hablar ahora y tener cierta incidencia en lo que hagamos sobre los despidos del pasado es precisamente

y como posicionamiento político de este parlamento ante prácticas que consideramos no aceptables

a despidos prematuros que se podían haber evitado perfectamente porque son empresas que reitero tenían el riñón forrado

y rascando algunos más en ayudas públicas cuando tienen un periodo de pérdidas inmediatamente recurran a despidos masivos

porque hay que tener corresponsabilidad corresponsabilidad una cosa y lo hemos dicho en multitud de ocasiones son empresas que realmente tienen dificultades fuertes

o porque esa empresa ha habido un problema particular y son empresas que realmente no hay por dónde cogerlas muchas veces y no hay por dónde salvarlas

coyuntural y estructural decía antes ez da soilik hitz kontu bat coyuntural tiene efectos jurídicos

coyuntural es no va a beber usted más agua hoy ni comer

a ver si vemos la diferencia y jurídicamente coyuntural es ajustes temporales y estructural es

gracias señora presidenta yo señor casanova

que ha comentado porque yo creo que demuestra que no se parte

en el que nos encontramos usted ha dicho que se permite al gobierno a ponerse de perfil en estos procesos

en una contradicción porque reconoce que sabe cuál es el marco jurídico en el que nos podemos mover en el ámbito de la actuación yo

con la sensación de que en algún aspecto

consciente de que además de las reuniones que hemos podido tener y de las que hemos participado con trabajadores y trabajadoras de estas empresas a través de las comisiones parlamentarias su grupo no es el único que se ha reunido con ellos yo le puedo asegurar que cada vez que nos hemos reunido con ellos y también se puede ir al diario de sesiones para ver

comisión les trasladé les traslade directamente el ofrecimiento de la mediación por parte del gobierno vasco

que el marco actual lo que exige es que las dos partes

ocasiones con los estibadores por ejemplo no se puede hacer la realidad es que hay un real decreto del año dos mil doce también

cuatro o cinco líneas que establece qué es lo que tiene que hacer la autoridad laboral ante un proceso de ere

es imposible porque ya lo que sería el permiso previo de la autoridad laboral ha desaparecido ha desaparecido

no existe no existe igual algo que tenemos que abordar

ámbitos no en esta cámara tengamos entre otras cosas que reformar cuando proceda ese real decreto del año dos mil doce yo creo que en ese aspecto estaremos de acuerdo elkarrekin podemos izquierda unida el partido socialista y unas cuantos partidos más de los que están en esta cámara otros

algunos puntos de acuerdo y el objetivo tendrá que ser incentivar la necesidad del acuerdo en todos esos procesos y en eso podemos estar de acuerdo pero el escenario

ese es el escenario que tenemos y yo quiero poner en valor la transaccional porque aquí se ha dicho que la transaccional más o menos

dice muy claramente que este parlamento entiende que ante la situación que vive el sector las medidas que deben adoptarse tienen que ser aquellas que permitan

y la adaptación de los nuevos retos del sector con el objetivo principal del mantenimiento del empleo y evitar la precarización de las condiciones laborales y a mí me parece muy importante que este parlamento diga esto sobre todo si estamos hablando continuamente

porque esto concatena con el empleo decente porque también la transaccional pone en valor la necesidad del diálogo social la negociación colectiva y el acuerdo

hemos hablado aquí llamamos a las empresas y a los trabajadores a que busquen soluciones alternativas a los despidos que permitan a estas empresas

considerando fórmulas coyunturales que eviten despidos y que permitan la readmisión de personas

y también llamamos al gobierno vasco a colaborar activamente para que se mantengan abiertas

para nada y por último por la parte industrial esta enmienda insta al gobierno vasco a seguir trabajando con el conjunto del sector con el resto de administraciones públicas

asumir los retos de consolidación competitividad arraigo formación

con el objetivo de mantenimiento del empleo y condiciones laborales dignas

cosa que me ha llamado también la atención nos ha sacado en la primera intervención ha sido

dice claro es que su enmienda no recoge esto no recoge y nos ha dado un listado pero es que yo me he ido a su enmienda y la suya tampoco tampoco habla de esas cuestiones

que es que en la enmienda transaccional este tipo de casos no se recogen

yo creo que ustedes hoy podrían haber firmado esta enmienda transaccional y que incluso podrían apoyarla no lo van a hacer nosotros creo que ponemos nuestro granito de arena y yo creo y le quiero reconocer al

la capacidad de acuerdo que ha tenido con nosotros gracias eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak bertatik arruabarrena jauna zurea da hitza

beraz no nos queda otra que persistir en las líneas de actuación para que en la recuperación tengamos la capacidad de producción

debemos solicitar la máxima responsabilidad a empresarios y trabajadores mientras trabajamos activamente en la consolidación del sector que otorgue al sector aeronáutico vasco

gracias de nuevo señora presidenta traemos hoy a esta cámara un tema importante para euskadi la imposición del euskera en la escuela

eliminación de la oferta del modelo a en el sistema educativo

porque es muy importante para muchas familias y para muchos niños vascos que viven esta anomalía como un grave problema que afecta gravemente a su escolarización

no son los que votan al nacionalismo pero son también ciudadanos vascos con los mismos derechos

y que también necesitan que traigamos aquí su voz y a pesar de ser un tema importante sin embargo es un tema del que se habla poco y del que apenas

que a lo largo de años y años de nacionalismo han conseguido acallar e ignorar las voces que lo planteaban

de que el problema no existe se vio muy claro cuando el consejero de educación hace pocas semanas en esta misma cámara me respondía a una pregunta de control sobre este mismo tema diciéndome que no me inventara problemas donde no existían

sino que se ignoran y se tapan porque eso no conviene a la agenda política del nacionalismo este fenómeno de acallamiento

han logrado que las propias víctimas las familias que no hablan euskera se hayan resignado y hayan aceptado que deben asumir la situación

porque entre otras cosas implica enfrentarse a los poderes públicos y al pensamiento político predominante

denunciarlo o reivindicarlo con el señalamiento que supone implica un grado de valentía y compromiso que pocas personas están dispuestas a asumir

porque no se puede pedir a todo el mundo que sea un héroe y más con lo que se ha vivido en el pasado en esta tierra se comprende muy bien que aun haya gente que en determinados entornos no quiera quedar señalada empecemos por ver lo que dice la ley al respecto

de diecinueve de febrero recoge en su artículo quinto que corresponde a los poderes públicos de la comunidad autónoma vasca

que deseen así como al desarrollo de los mecanismos administrativos que garanticen la libertad de elección repito que garanticen de elección la citada ley en su artículo veintiuno establece con claridad que el departamento de educación universidades e investigación

teniendo en cuenta la voluntad de padres o tutores y la lingüística sociolingüística de cada zona

este párrafo legal ha sido la rendija que ha dado cobertura a la exclusión sistemática y estructural del derecho a estudiar en español en euskadi

se ha ido poco a poco construyendo una situación lesiva para muchas familias vascas que no tienen en sus centros educativos una oferta activa y real para elegir el modelo a

en el que los padres deben señalar el modelo elegido se ha incluido por ejemplo un parrafito que dice literalmente al inicio del curso diecinueve veinte por ejemplo en la franja de tres a cinco años el modelo quinientos es el mayoritario y sigue creciendo sube siete décimas

y el modelo a por su parte es la opción lingüística elegida por el tres coma cinco por ciento de las familias esto es una forma diría que nada sutil

e influir en la decisión de las familias a las que se les está diciendo

están eligiendo para sus hijos una opción minoritaria marginal y socialmente señalada

y determinado partido no llegó al diez por ciento de los votos pero con la diferencia de que el voto secreto y no tiene consecuencias

durante todo el tiempo escolar esto es inadmisible porque es muy poco democrático y con este mecanismo y otros parecidos

el noventa y tres coma uno por ciento de los municipios de álava y el noventa y siete coma tres de los municipios de gipuzkoa no tienen oferta pública de modelo a

pero no a costa de sacrificar otros criterios como la cercanía o que tengan que ir a otro municipio a estudiar por tanto la oferta

y por tanto el argumento que utiliza sistemáticamente el gobierno vasco de forma reiterada de que se trata de la elección de los padres es completamente falaz pero la ley lo dice muy claro

y cuál es la realidad sociolingüística pues según datos del propio gobierno vasco encuesta sociológica realizada por el observatorio vasco de la juventud del gobierno vasco el ochenta por ciento de los jóvenes vascos tienen el español como lengua materna

solo hace falta ver en qué idioma hablan los chicos y chicas cuando salen del colegio en qué idioma

o cuál es el idioma que utilizan para relacionarse entre ellos cuando realmente pueden elegir de acuerdo con este dato el ochenta por ciento de los colegios al menos deberían tener modelo a

y su sentido y a la vez se repite una y otra vez un argumento tan manipulador y falaz

se dice que se trata de garantizar el derecho a estudiar en euskera

en la enmienda de bildu no es verdad que obligar a alguien a hacer algo quitándole todas las alternativas de elección sea garantizar ningún derecho por muchas veces que se repita esta falacia no se convierte en realidad aquí todo el mundo tiene derecho a estudiar en euskera

porque todos los colegios ofrecen esa posibilidad a lo que algunos no tienen derecho

eso es imponer el euskera obligatorio una actitud completamente totalitaria que lleva años sufriendo una parte de la sociedad vasca imponer un idioma

que hay dos cosas que no se deberían hacer nunca con un idioma prohibirlo e imponerlo porque al imponerlo se produce una reacción natural de rechazo que explica por ejemplo porque ha retrocedido el uso del euskera en la sociedad durante la pandemia cuando los mecanismos de imposición en la escuela se han reducido

que debemos cuidar y proteger pero imponerlo no es más que una torpeza fruto de un reflejo totalitario que atenta contra el propio idioma así que por favor por el propio euskera dejen de imponerlo porque además su imposición está entre los factores que explican los malos rendimientos académicos de muchos alumnos

haciendo que las materias sean mucho más difíciles de lo que podrían ser un reconocido experto como paco luna el director del isei ivei en una entrevista recientemente publicada decía al respecto es un poco largo pero merece la pena

decía que los modelos bilingües desde que se implantaron en los años ochenta han funcionado suficientemente bien

en cuanto a recursos formación o materiales pero ahora en cierta forma dice podemos decir que casi hemos llegado a la estación de llegada de los modelos lingüísticos es decir llegar

que según todos los datos es el único que ha dado resultado en euskaldunizar al alumnado

hace algún tiempo en este momento cuando según nos indica la evaluación de diagnóstico del dos mil diecisiete

no tiene suficientes competencias en euskera que recordemos que es su lengua de aprendizaje entonces ya no lo podemos definir ya no lo podemos afirmar tan categóricamente

ha cambiado completamente el modelo quinientos no es el modelo quinientos que hemos tenido durante muchos años ahora en el sector público todo el alumnado está

y sigue diciendo quizás no somos suficientemente conscientes de que este modelo se describe por tres características primero

que es el instrumento de trabajo más importante de un docente y tercero

no pueden ayudar plenamente a sus hijos porque desconocen la lengua de instrucción

además ponemos a todo el alumnado a instruirse en una lengua muy alejada lingüísticamente de la lengua predominante

dice este experto es como si nos propusiéramos que todo el alumnado del país vasco aprendiese alemán

para todo el alumnado sin ningún tipo de distinción ni separación porque ese es nuestro objetivo social y lingüístico no hemos adoptado un criterio como en algunos casos se asumió de hacerlo por zonas sociolingüísticas

hasta aquí la cita del experto ya sabemos que debajo de todo esto hay un proyecto otra vez de construcción nacional perfectamente armado

aunque el coste sea que haya que dejar de lado a buena parte de la sociedad vasca es un coste que se da por asumido y por amortizado y hay que reconocer que esto lo han hecho bien a largo plazo y con rigor cosa que por cierto no se ha sido capaz de hacer en el resto de españa durante el periodo democrático desde el setenta y ocho se han sucedido muchas cosas buenas en este país y el balance creo que es muy satisfactorio

que no hemos entendido la educación como una cuestión de estado los nacionalistas sin embargo esto lo han tenido muy claro desde el primer día

han conseguido que desde el establecimiento de este sistema hayamos pasado de dos tercios de alumnos que estudiaban en modelo a a la lamentable situación actual por todo esto

a que la oferta del modelo a se convierta en real y efectiva en la educación vasca

o concertado vasco si un solo alumno lo solicita y a que se invierta la misma cantidad de recursos en la promoción del modelo a que en el resto de modelos

gracias señora presidenta buenas tardes de nuevo a todos

décadas arrastrando un problema que además pasa por la gran mentira de los modelos lingüísticos y por la deriva totalitaria y francamente perniciosa de exigir el pe ele dos a todos los profesores la educación pública debe garantizar un nivel muy alto de conocimiento del español al terminar la etapa obligatoria pues el nivel de competencia de un idioma no se garantiza única y exclusivamente hablándolo en la calle un estudiante español viva donde viva debe terminar la eso teniendo un conocimiento muy alto de la lengua principal de españa

en este debate tampoco podemos obviar lo gravemente perjudicial que es para nuestro sistema educativo limitar el número de profesores que puede dar clases en los centros de enseñanza ya que les obligan a conocer un idioma que no es el prioritario

esto no les importe he leído en la justificación de pp ciudadanos que la situación actual es perniciosa para el euskera porque lo impone y eso produce rechazo pero señor gil no solamente es esto que también estoy de acuerdo con su iniciativa y además votaré a favor pero la cuestión

con la justificación de una nación imaginada que tiene como fundamento la lengua han impuesto

reparto de ingentes cantidades de euros en euskaldunizar y aquí es donde está el quid de la cuestión

así sea una injusticia para nuestros jóvenes que terminan pasando por la educación pública sin ser competentes en ninguna de las dos lenguas así sea un golpe letal a la calidad del profesorado que debe hacer esfuerzos mayúsculos en aprender un idioma para la burocracia y no en mejorar en la docencia de sus asignaturas los argumentos son muchos y muy variados pero dado el tiempo de que dispongo me centraré en uno

el español es nuestra mayor riqueza nos abre la puerta a un mundo de más de cuatrocientos millónes de hispanohablantes nos confiere la posibilidad de poder vivir pudiendo comunicarnos con gente de todo tipo y de muchos puntos

estas virtudes se traducen en poder en beneficios que no tienen otras naciones y que no podemos despreciar

cual sea les pido que eduquen en español por sus hijos por nuestro futuro y por el suyo hablemos español eskerrik asko

legebiltzarkideok sailburua arratsalde on guztioi en cuestiones de cultura y de saber solo se pierde lo que se guarda

y es que en cuestión de idiomas lo que tenemos que hacer es dar dar y dar y como madre migrada con el castellano como lengua materna tengo que decir que me siento muy orgullosa de que nahia y elene hayan crecido

que sean y se sientan euskaldunes y que incluso se manejen en inglés casi mejor que yo en euskera

eta eskola publikoaren legean hablemos de modelos que sumen y no de iniciativas que resten eta hori ez diot nik

sozialari no perdemos nada y ganamos mucho sumamos idiomas y les ayudamos a formar parte de esta sociedad a sentirse vinculadas a la cultura e identidad local lo van a ver y vivir en su entorno

forman parte de nuestra identidad por lo tanto saber euskera ayuda a entender vivir relacionarte y desarrollarte en esta sociedad y se lo digo por experiencia

mucho más enriquecedora positiva y sobre todo que ayuda a la cohesión social

vivimos en un mundo volátil incierto complejo ambiguo

se aplica al mundo educativo y en este mundo en el que se encuentra el sistema educativo vasco con cuarenta años de competencias plenas en educación que partiendo de una situación muy frágil y débil ha sido capaz de levantar un sistema de educación bilingüe y esto yo creo que tiene varios agradecimientos pendientes lehengo eta behin

y aunque se han conseguido logros importantes en este campo es hora ya de repensar y de reformular los modelos lingüísticos nuestro sistema presenta graves problemas de inequidad interna y situaciones graves casi escandalosas de segregación

y la inversión de educación en euskadi parece no ser suficiente ni eficiente si observamos los resultados en evaluaciones externas

y el reparto de responsabilidades no es equilibrado ez dezagun inoiz ahaztu kohesio sozialak duen garrantzia

desio duen etorkizuna por todo ello desde elkarrekin podemos izquierda unida apostamos por la superación del actual marco de modelos lingüísticos

no euskalduniza y no responde a las demandas de la sociedad actual queremos por tanto un nuevo marco que se adapte a la nueva realidad apostamos por un modelo trilingüe pero con el euskera como eje vertebrador

del proyecto educativo lingüístico de cada centro un modelo que garantice que al acabar la enseñanza obligatoria el alumnado sea competente para comunicarse en euskera y en castellano tanto de forma oral como escrita además también tenemos claro que

es decir no aprender la lengua sino aprender cosas en esa lengua

de cara a conseguir objetivos marcados y por último que se dispongan los instrumentos necesarios para garantizar la oferta universal y la gratuidad para aprender euskera

desde elkarrekin podemos izquierda unida creemos que lo realmente importante es avanzar hacia escuelas sin segregación ni de carácter social

ni lingüístico tenemos claro que no queremos políticas educativas ni lingüísticas que excluyan eta

ekarriko ditut hona simil bat da que es muy gráfico con terminología de hoy en día describía así el gran fallo de los modelos y decía imaginemos que se dispensan tres vacunas la a cura solo al cinco por ciento la b al treinta por ciento

hasta a un ochenta por ciento no tiene sentido mantener tres medicinas distintas cuando solo una ofrece buenos resultados

el gran fallo del sistema educativo ofrecer un tratamiento a que apenas cura y tiene toda vocación de tirita eskerrik asko

y qué pereza su propuesta su propuesta de hoy y la defensa que ha hecho de ella es una fake new en toda regla de la a a la z

ha contado usted aquí hoy una realidad que no existe

lo dice usted que los modelos lingüísticos actuales han dado pie a una exclusión sistemática y estructural del derecho a estudiar en español falso

falso como diría como diría precisamente su exjefe actual lo escuchan

es el silencio porque ni una sola familia ni un solo alumno alumna ni un solo alumne se ha quedado sin conseguir la competencia lingüística en castellano en este país ni una sola persona en este país

dice usted también que durante décadas en euskadi se está utilizando el sistema educativo para imponer el euskera a niños y familias que de forma natural no lo utilizan falso falso durante décadas durante décadas lo que se ha intentado con la implantación de los modelos lingüísticos

en los dos idiomas oficiales de nuestro pueblo por ley cosa que por cierto cosa que por cierto no se consigue pero con el euskera no con el castellano por lo tanto falso dice usted que el euskera

de algo nocivo falso también falso estudiar un idioma o dos o tres o cuatro nunca

para nadie y no hay ningún estudio tráigalos no hay ningún estudio que diga que el aprendizaje de idiomas es nocivo para nadie dice usted también

que podrían también considerarse los motivos pedagógicos que han sido suficientemente estudiados al parecer que esos aprendizajes se produzcan en la lengua materna dice usted

falso los mejores resultados en el sistema educativo vasco los mejores resultados en las pruebas diagnósticas los mejores resultados en pisa y los mejores resultados en la selectividad

en euskera es más para que lo sepa usted atienda para que lo sepa usted en dos mil dieciséis en dos mil dieciséis en el estado francés

quién fue qué centro fue el que sacó de media la mejor nota en la selectividad francesa pues en concreto

etxepare los alumnos las alumnas los alumnes que estudiaron única y exclusivamente en euskera sacaron la mejor nota de todo el estado francés

a pocos nos la cuela y vamos a hablar claro porque hay que hablar claro esta propuesta que usted nos ha traído hoy esta propuesta muy lejos de intentar mejorar el sistema educativo de araba bizkaia y gipuzkoa lo que busca

porque su propuesta y hay que decirlo claro y lo digo claro lingüísticamente hablando quiere acabar con el euskera es una propuesta lingüísticamente

al euskera bajo la excusa bajo la burda excusa de la libertad de elección de las familias

un poquito de rigor porque esto esta historia que usted hoy nos trae aquí ya nos la conocemos cuando la asamblea francesa la asamblea francesa abre la puerta a la ley molac

ipar euskal herria sale la ultraderecha francesa y la recurre pero cuando aquí al lado en nafarroa el gobierno del cambio abre la puerta al modelo quinientos en las escuelas públicas del sur de nafarroa sale también toda la derechona rancia

y aquí donde no hay ningún problema por mucho que usted nos lo dibuje donde no hay problema de convivencia entre modelos más allá de lo que ha nombrado la señora de elkarrekin podemos izquierda unida ustedes buscan lo mismo que es aislar al euskera acabar con el euskera pero para que lo sepa todos los datos así lo demuestran el modelo a tiene los días contados porque el modelo además de ser discriminatorio además de ser segregador

en euskera además de todo eso afortunadamente y no voy a hacer comparaciones con ningún tipo de representación parlamentaria afortunadamente el modelo a es residual en araba

qué le voy a decir ubíquese ubíquese en la realidad en la que vivimos ubíquese y atienda a las demandas de la sociedad

a esta propuesta que por cierto es reiterativa absolutamente repetitiva ya prácticamente hasta el cansancio porque no sé las veces que habremos tratado este tema en las sucesivas legislaturas en este parlamento creo que la cifra

hasta ahora venía por parte del partido popular de upyd

ciudadanos pero en fin sea cual sea el protagonismo de la iniciativa

más allá del efecto propagandístico que ustedes puedan conseguir que creo que va a ser realmente poco al inicio de la andadura autonómica se pusieron en marcha los modelos lingüísticos de la escuela el modelo a básicamente castellano modelo b

de la etapa educativa los alumnos pudieran desenvolverse con soltura en cualquiera

euskera y castellano porque los dos son idiomas oficiales

al castellano como lengua vehicular tendrán que tener en cuenta

como lo es el gallego en galicia y como lo es el catalán en cataluña ambos son lenguas vehiculares en cualquier caso el

porque basándose en la elección de modelo lingüístico por parte de los padres aunque esté lo quiere rechazar así ha sido a partir del ochenta y tres

del modelo lingüístico qué ha ocurrido que en la práctica ha ido ganando alumnos de forma natural

hasta el punto de que solo el tres por ciento de los niños que acceden a la educación con tres años eligen el modelo exclusivamente en castellano

igual que el euskera el setenta y nueve coma cuatro de los niños en educación infantil cursan íntegramente en euskera el señor gil en su iniciativa hace referencia el castellano como lengua vehicular

con la aprobación de la nueva ley de educación pero quiero decirles que ese concepto de lengua vehicular en las leyes educativas no había aparecido nunca ni en las leyes educativas impulsadas por el pp ni en las leyes educativas impulsadas por el partido socialista

y ha vuelto a desaparecer afortunadamente en la ley educativa que actualmente está vigente la llamada ley celaá en cualquier caso creo que es bueno recordar

con el pp en el gobierno el gobierno vasco llegó a un acuerdo con el ministerio de educación para dejar el sistema de modelos lingüísticos vigente en euskadi a salvo de la aplicación

y el gobierno vasco que la legislación autonómica garantizaba el bilingüismo en una proporción razonable eso no fue un gobierno rojo bolivariano ni un gobierno separatista fue un gobierno del partido popular

una oferta educativa sostenida con fondos públicos que permite estudiar con el castellano como lengua vehicular unos años antes con el gobierno del lehendakari patxi lópez se introdujo en el sistema educativo una tercera lengua

en lo que se llamó trilingüismo que comenzó su andadura por cierto con cierta polémica por algunos actores que entendían que la introducción del inglés perjudicaba

en concreto fue el sindicato steilas quien recurrió a los tribunales el establecimiento de esa tercera lengua

respaldó la propuesta por el trilingüismo en el currículum vasco es bueno recordar nuevamente vuelvo a repetir que existen dos

el euskera y el castellano y que es la primera de ellas el euskera

es verdad y eso es bueno sin que esto haya supuesto en ningún momento la desaparición del castellano

de uso habitual ni ha supuesto ni va a suponer no va a desaparecer el castellano en la comunidad autónoma vasca se va a seguir usando

primero por parte del pp después por upyd y ahora por ciudadanos en presentar una situación de práctica desaparición del castellano en euskadi que está muy lejos de la realidad mientras que es cierto y eso es cierto que el modelo quinientos de enseñanza en euskera se encuentra ahora ante un nuevo desafío el último

mejorar la comprensión lectora en nuestra lengua y por ende mejorar las competencias de sus alumnos tampoco es cierto que no exista la posibilidad de elección de modelo lingüístico otra cosa es que de forma natural las familias vascas se han ido inclinando progresivamente

especialmente en este último y yo no percibo en la sociedad

con el que usted plantea el problema cuando sale a la tribuna no existe habrá determinados elementos determinados sectores determinados grupos que lo sientan así pero eso no es un sentimiento mayoritario

no se despierta esa sociedad agobiada porque vaya a dejar de hablar castellano le van a impedir usarlo en la sociedad vasca no es cierto este aspecto por cierto el de que existe una libertad de elección que responde a la voluntad de los padres

y nosotros nos ratificamos en la respuesta a aquella pregunta nosotros entendemos que el castellano como lengua cooficial de euskadi no corre ningún peligro de desaparecer señor gil ninguno y que si se han reducido aulas de modelo a

en la enmienda de totalidad que hemos presentado con el partido nacionalista vasco apostamos por seguir asignando los modelos lingüísticos teniendo en cuenta la demanda de las familias de acuerdo con la libertad de elección y la situación socioeconómica lo que usted ha leído antes

y financieros en cualquier caso nuestra filosofía es promover un modelo educativo basado en el trilingüismo desde la base bilingüe euskera y castellano y si pudiera ser posible introducir un cuarto idioma por ejemplo el francés tampoco sería malo

supone una riqueza supone un enriquecimiento personal y un factor de progreso y de calidad del ser humano que es capaz de aprender cuantas más lenguas

valoramos positivamente el beneficio que supone para los alumnos conocer más de una más de dos o más de tres lenguas y si lo conseguimos seremos una sociedad mucho mejor preparada

implantar el modelo a en cualquier centro público concertado vasco invertir misma cantidad de recursos en la promoción del modelo a que del resto de modelos sin orientar la elección de las familias luego no hablamos de libertad de elección hablamos de implementar

más allá de lo que las familias en euskadi lo deseen o lo requieran hau da ekimen honen benetako arrazoia euskara gutxiago

al comenzar su intervención ha hablado de imposición

si recogemos o recordamos cuáles son las funciones del departamento entre muchas de ellas está una que el propio señor gil ha mencionado que es la planificación de los modelos

con el fin efectivo del derecho de padres madres y alumnos a elegir los modelos que deseen así como el desarrollo de los mecanismos administrativos que garanticen

y desde su aprobación desde hace veintiocho años este gobierno ha trabajado está trabajando y seguirá trabajando para garantizar este derecho conforme

ekimena horretaz zihoan las familias eligen el modelo que consideran más adecuado para sus hijos e hijas ejercen su derecho a la elección y mayoritariamente

un cambio de actitud y yo también de corazón tras escuchar hoy su intervención le propongo que abandone

no hablamos de ideologías el euskera es un bien común lo ha dicho usted mismo denona da gure kulturak duen altxorrik baliagarriena da aberastu egiten gaituena

euskadiko errealitatea hau da gure errealitatea los y las jóvenes vascas hablan castellano sí pero quieren estudiar en euskera quieren estudiar en euskera

barneratuz y aquí está esta humilde parlamentaria que ha estudiado desde infantil

debatiendo aquí con ustedes en euskera y en castellano y eso no les parece maravilloso no son capaces de ponerlo en valor es inconcebible

señora gonzález primero oponerse a la imposición de algo no es restar oponerse a la imposición de algo es

y estoy de acuerdo en todas las cosas que ha dicho respecto a las muchas ventajas que tiene el aprender euskera si no lo dudo si he sido el primero en decir que creo que el euskera es un tesoro y lo creo realmente pero

es que lo que estamos diciendo es no a la imposición del euskera no no al euskera ustedes me han llamado euskalfóbico y no sé cuántas cosas más que no que se están equivocando conmigo

a otras intervenciones yo no sé si de legislaturas anteriores pero

pero que el euskera no creemos que se deba imponer por el propio bien del euskera incluso

hablan de cohesión social porque cohesión social significa que todo el mundo tenga que creer lo mismo y hacer lo mismo

y claro y puede que haya gente que no quiera aprender euskera o tienen que aprenderlo a la fuerza es decir si estamos de acuerdo en que la gente que quiere aprender euskera no tiene ningún problema pero el problema es que no tienen capacidad de elección

de acuerdo esto que ha dicho usted de que el modelo a se convierte en el gueto de las élites y de los pobres

bueno supongo que luego me lo explicará mejor porque la verdad es que no lo he entendido bien y me parece una barbaridad

aprender euskera es curar la vacuna que cura y por tanto no aprender euskera es estar enfermo pero de qué estamos hablando

el señor arrese me parece bien que a usted le parezca esto una lata y que le dé pereza

porque volveremos a hablar de esto mucho más vamos a hablar de esto

porque creemos que es un tema importante que tenemos que defender y bueno ya veo por sus insultos por su tono por sus gritos entiendo que es un tema que les ofende y que les duele lo lamento porque no es este nuestro objetivo esta no es una propuesta contra nadie eh

y por supuesto no es una propuesta en absoluto contra el euskera es una propuesta

la capacidad de elección y por lo tanto estamos convencidos de que aprender un idioma señor pastor claro por supuesto

otra cosa es cuando nos obligan a aprender un idioma esto es otra cosa distinta

cuantos más mejor pero no a la fuerza por favor no a la fuerza no nos preocupa la desaparición del español claro que no lo que sí que nos preocupa es que no haya

de elección esa es la cuestión y bueno por supuesto que creemos que hay que garantizar

claro que sí pero por favor siempre y cuando no se imponga nada que esta es la clave

en que haya verdadera capacidad de elección y para que haya capacidad de elección tiene que el modelo en los colegios si no está no hay capacidad de elección real

de acuerdo mire nosotros queremos un modelo a con una asignatura en euskera que se dé bien

pero con una asignatura en euskera y un modelo a y un modelo b y un modelo quinientos

sino que además de aprender el idioma la gente es capaz de aprender los contenidos de matemáticas en física etcétera y que no se convierta en un problema porque entonces se produce un rechazo natural

creo que merece el mismo respeto que el que traen ustedes y a veces a nosotros no nos gusta empezando por ahí

esto no es priorizar el euskera frente al español yo creo que sí no están en el mismo nivel

intervino el señor gordillo y la presidenta se dirigió a él en euskera cuando él no entendía el euskera no es excluyente el euskera en esta cámara claro que lo es

y le voy a decir por qué porque se está perdiendo y desdibujando porque hay muchas personas que ya hablan de idioma idiomo idiome

señor gil yo no vengo aquí a hacer ningún anuncio de ningún euskaltegi

de elección y he elegido un modelo que me parecía lo más justo pero igual que yo

que son la cantidad y cantidad de familias

un modelo un modelo que nos iguala que iguala

que igual no está llegando a tener los resultados que todas queríamos pero que desde luego ha hecho lo que no se ha conseguido en otros sitios con lenguas minoritarias

sin duda sin duda de lo que estamos hablando estamos hablando de los centros privados de los centros concertados de esos sitios donde se ha utilizado ese modelo precisamente para proteger a esas élites y hacerles

o las otras las de la pobreza lingüística

a las que esa imposición de ese modelo que usted reivindica hoy aquí también les lleva a una pobreza y bueno sin más no voy a darle más tiempo porque sé que también es verdad están en campaña y estamos en un momento en el que

dicotomía sobre pública concertada

comunismo libertad socialismo libertad

y la última la última diversidad libertad un estudio que ha salido

porque es muy interesante y que habla de la segregación escolar eskerrik asko

en esta segunda ronda me quiero dirigir a las familias que tienen que elegir modelo lingüístico

que hizo en bilbao en uno de sus primeros actos como miembro de euskal herria bildu sería en el dos mil dieciséis más o menos

a estudiar euskera y yo también quiero invitar a esas familias que igual dudan en qué modelo matricular a su hijo o a su hija o a su hije les quiero invitar a que se matriculen en el modelo quinientos en el modelo en euskera porque les va a abrir

un mundo lleno de posibilidades un mundo donde tienen libros e historias infinitas increíbles lleno de canciones y de letras maravillosas

con una ventana de oportunidad moderna que mira hacia adelante y que nos abre las puertas al mundo el del euskera bigarrenik

yo creo que hemos intentado hacerle ver cuál es la realidad aquí en euskadi en este país pero no hay más sordo de quien no quiere oír

se ejerce ese derecho se ejerce aquí en euskadi desde hace más de veintiocho años es una voluntad y real de las familias vascas que apuestan mayoritariamente por elegir el modelo

aunque lo niegue es una realidad es una realidad y simplemente quisiera terminar mi intervención de hoy ba legebiltzar honetako